en dos mil doce tanto la economía española como la de la zona euro

la economía francesa en fin se halla estancada en la segunda mitad del año

hablamos de nuestros dos principales socios comerciales más allá del propio estado español en este contexto las estimaciones de evolución de nuestro entorno para los próximos años han ido corrigiendo significativamente a la baja las expectativas de crecimiento económico corrección

para el año dos mil trece y ha afectado a todos los países de la unión europea evidentemente esta evolución esperada de nuestro entorno condiciona las previsiones económicas para los próximos años de tal manera que la economía vasca seguirá una trayectoria similar a la descrita para el conjunto de la unión europea este año dos mil trece nuestra economía se registrará una caída de su actividad análoga a la que ha presentado el pasado dos mil doce de manera que el crecimiento negativo de nuestro pib se situará en el en tasa interanual el empleo por su parte aunque de forma más atemperada que el año pasado seguirá cayendo a una tasa anual

lo que supondrá la destrucción de aproximadamente unos diecinueve mil puestos de trabajo y el aumento de la tasa de paro

el trece coma cinco de nuestra población activa por tanto las perspectivas para el año que acabamos de iniciar no son buenas y la salida de la crisis se retrasa al menos hasta finales del año dos mil catorce porque en efecto la recesión se ha acentuado

y sin embargo los últimos datos conocidos esta misma semana

y nos inducen a pensar el trimestre pasado o este primero de dos mil trece hemos tocado o estamos tocando fondo lo que dará paso ojalá así fuera

es decir a pesar del paulatino empeoramiento no es menos cierto que el ritmo de aceleración de la caída se ha ido atenuando así los trimestres anteriores el descenso de la actividad se cifraba y cinco décimas pero en el último cuarto trimestre del ejercicio pasado la pérdida se ha constreñido a dos décimas no obstante señorías les prevengo sobre la volatilidad a que se hallan sujetas

como la actual caracterizada por la persistencia de numerosas incertidumbres o en fases que apuntan

como también hice mi primera comparecencia ante la comisión correspondiente de la cámara considero oportuna una acotación previa antes de avanzar en este apartado

las principales leyes reguladoras se hallan pendientes de actualización o renovación concierto económico la ley de cupo y la ley de aportaciones luego

una reflexión sobre ello para qué una reforma fiscal en el entendido

en opinión del gobierno el objetivo debe ser doble primero posibilitar la suficiencia financiera del conjunto de instituciones de euskadi gobierno

a fin de garantizar las prestaciones de los servicios públicos básicos y esenciales y en segundo lugar una reforma para impulsar la actividad económica

a partir de ahí los ámbitos en los que la actuación de las instituciones vascas pueden actuar

las figuras de la imposición directa y la lucha del fraude fiscal a lo largo de esta mañana se ha hablado por diferentes grupos parlamentarios

poner en valor el trabajo institucional que diferentes instituciones

han realizado ayer mismo tuvo lugar un consenso importantísimo

pero durante estos últimos años las haciendas forales vascas

importante tenemos que poner en valor lo que las instituciones de este país han trabajado estos años de hecho el sistema tributario vasco hasta mediados del año dos mil nueve

ha dado validez al funcionamiento y a las actuaciones de todas las administraciones públicas señorías voy a poner un ejemplo muy grafico el año dos mil ocho

cuando evalúa la situación financiera del sector público local estatal se ve gráficamente

del estado residen en los municipios vascos el veinticinco por ciento y estamos hablando solamente de doscientos cincuenta y uno municipios de la comunidad autónoma de euskadi

con eso qué quiero trasladar quiero trasladar el mensaje de que el sistema tributario vasco ha dado garantía ha dado estabilidad ha dado suficiencia y

deriva fundamentalmente de la caída de la actividad económica en primer lugar y en segundo lugar este gobierno se encuentra también este gobierno

o de bildu se encontraría en la misma situación de una disminución de ingresos por la caída de la actividad económica en setecientos millónes y por la aplicación de las reglas de juego de estabilidad presupuestaria y marco presupuestario con un objetivo de déficit menor

en aproximadamente quinientos millónes decía señorías que el fraude fiscal

las haciendas forales de nuestro país están plenamente integradas conectadas y en colaboración permanente entre ellas también con la hacienda en navarra y con la agencia tributaria del estado

en junio del año dos mil siete a efectos de la conexión e intercambio de datos

y la agencia tributaria del estado en materia de lucha contra un impuesto en el que se produce mucho fraude como es el impuesto sobre el valor añadido los convenios que tienen las tres haciendas con la tesorería general de la seguridad social con el ministerio del interior

intercambiar información a efectos de desarrollar políticas subvencionales sectoriales que realizan los diferentes departamentos y que contrastan sus datos con las haciendas forales

por parte de las instituciones vascas decirles también que cuando hablamos de la revisión de los principales tributos hablamos de los tributos de la imposición directa

el gobierno quiere establecer los tres principios políticos que a su juicio deberían sustentar una eventual reforma tributaria

y sea de aplicación al conjunto de la comunidad autónoma de euskadi una reforma desde el más escrupuloso respeto a los ámbitos competenciales de todas y cada una de las instituciones y una reforma que se materialice mediante el acuerdo político e institucional desde estas premisas el gobierno en la medida de sus competencias

lo más amplia posible de carácter estructural equilibrada en el sentido de aunar de forma inteligente la suficiencia recaudatoria y el impulso a la actividad económica y equilibrada también en cuanto a su equidad y progresividad

y armonizada en este sentido señorías

al gobierno y en concreto al departamento que dirijo a través del órgano de coordinación tributaria no escatimaremos ningún esfuerzo para que dicho órgano sea un foro de encuentro un foro en el que converjan las iniciativas tanto de las instituciones forales como de las instituciones comunes en aras a la evolución y progresión de nuestro modelo impositivo conjunto

en relación a la situación de las leyes nucleares reguladoras de nuestros ingresos públicos y específicamente

porque señoras y señores parlamentarios el hecho de que euskadi tenga

de carácter general propio deviene directamente de la existencia del concierto económico por ello en tanto que el concierto económico constituye uno de los principales activos de nuestro autogobierno debemos esforzarnos en su permanente actualización

a las cambiantes circunstancias de la política fiscal para evitar que pierda sus potencialidades así como para que pueda cumplir su finalidad de garantizar la suficiencia financiera del conjunto de las instituciones vascas gobierno diputaciones y ayuntamientos si acudimos a las previsiones del propio concierto su modificación actualmente resulta perceptiva pues se trata de incorporar las nuevas figuras tributarias creadas por el estado

el impuesto sobre actividades de juego aprobado en mayo del dos mil once y todavía no concertado los nuevos impuestos aprobados el pasado año dos mil doce

de carácter nuclear el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito

sobre los premios de determinadas loterías y apuestas la modificación del punto de conexión de los impuestos especiales para incorporar dentro de los mismos

de ventas sobre minoristas de determinados hidrocarburos y finalmente la concertación de próxima aprobación de un impuesto que también se ha anticipado por algún otro portavoz parlamentario relativo al impuesto sobre transacciones financieras además de estas necesarias modificaciones

a la que me refiero también exige una revisión de su contenido para su puesta al día en cuestiones que todavía están pendientes de desarrollar y profundizar en su contenido como son

de renovación relativos a la junta arbitral y a la comisión de coordinación y evaluación formativa

para que entre otras cosas las instituciones vascas conozcamos con la suficiente antelación los proyectos normativos del estado que requieran adaptaciones del concierto

primera cuestión que también vale para el representante del partido popular porque ha sido recurrente y casi el único soporte de su intervención frente al partido socialista mírenme

no he gobernado en españa no he propuesto ninguna reforma fiscal contraria a lo que estoy defendiendo aquí vale

es más no lo digo ahora por oportunismo lo dije también en su momento

en las actas de este parlamento hay principios que no cambio y me opuse y me opongo a algunas de las modificaciones fiscales hechas por el gobierno socialista de españa es más dije en su momento que creía que algunas de ellas eran contrarias

de izquierda creo que fueron un grave error cargar contra funcionarios y pensionistas y por ejemplo no aumentar la presión fiscal a los que más tiene en este país

puedo empezar a hablar ahora ya de lo que nos ocupa aquí

durante tres años tres años reclamando justicia social en los impuestos tres años queriendo

para ayudar a la economía productiva de este país para sostener los servicios y las prestaciones públicas tres años queriendo hacer un país mejor

que nos deben los que se han opuesto a todo esto no al gobierno socialista a euskadi a la sociedad vasca porque ustedes quisieron que le gobierno anterior no tuviera recursos

para ahogar al gobierno socialista para que no tuviéramos más remedio que hacer recortes para que no pudiéramos atender a las necesidades y a las urgencias de la sociedad vasca

absoluta sí son ustedes los responsables de que no se hiciera la reforma fiscal porque ustedes gobernaban en aquel momento las tres diputaciones forales las tres y

el que es hoy lehendakari dijo el año pasado que eso de decir que los que más tienen pagan más era pura demagogia el que ahora es consejero de economía rechazó organizar un pleno de fiscalidad porque decía que se parecía más a una jornada de reflexión

calificó de ocurrencia la propuesta de la reforma fiscal el diputado

dijo que una subida de impuestos provocaría deslocalizaciones y que no eran más que cosas izquierdosas ahora sí poco después él hizo una reforma presentó un nuevo impuesto de patrimonio que además alardeó de que nos pasaba por la izquierda

lo que ha pasado de verdad en este país esto es lo que ustedes han impedido reformar y cambiar en euskadi

en su línea habitual a ver como ridiculizo sí sí a ver como ridiculizo a los demás para no mojarme ni cuando llueve a ver si alguna vez aporta algo

porque ha empezado diciendo algo ya demoledor este es un debate viejo irreal e inútil no hay nada más nuevo

a los ciudadanos como la que ustedes quieren imponer que intentemos evitarla

no hay nada más real que enfrentarse a los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas con recursos suficientes para hacerlo no con frases ocurrentes no con recursos

que una herramienta como es la fiscalidad que se pone al servicio de la igualdad de la solidaridad y de la justicia en este país del progreso eso es lo que estamos haciendo también con este debate viejo irreal e inútil lo que ha sido ha sido su intervención que no aporta absolutamente nada a lo que estamos discutiendo aquí y habla

el que quiere cambiar las cosas allí donde se abre la posibilidad para hacerlo que es lo que ha hecho el partido socialista o quien no quiere tocar nada el que prefiere que todo esté

ustedes que han querido mantener un sistema fiscal

la fiscalidad en este país y por cierto con eso lo que hacen es marginar

de ciudadanos que entran en desigualdades manifiestas la

estas cosas luego dice no se enteran es que la cuestión es que hay menos ingresos porque

esta no es una cuestión coyuntural esto no lo traemos aquí porque haya crisis esto es una cuestión estructural de país un país lo decía antes justo necesita una fiscalidad justa y la nuestra

y la queremos cambiar con crisis o sin crisis este no es un asunto coyuntural para ver cómo tenemos algunos recursos más

usted quiere el modelo del país al que lleguemos a través de los recortes de las privatizaciones de menos derechos no ese no es el mío el mío es radicalmente contrario mire yo cuando miro ya salió aquí

sí yo quiero sus servicios yo quiero esas prestaciones

yo también tengo que querer lo siento la misma presión fiscal para poder hacerlo posible

con algunos países por debajo porque los impuestos que se han subido aquí

los que el gobierno de mariano rajoy con el iva nos ha impuesto los más injustos

el de patrimonio que algunos a arrastras han tenido que asumir y luego vuelve a las empresas dibuja el panorama

empeorará si subimos el impuesto de sociedades y ahí es donde otra vez se vuelve a retratar intentando engañar

lo he dicho antes y lo repito primero igual lo que había que hacer era cambiar el nombre

de las empresas es decir no afecta

es que el empresario se lleve todo el beneficio crudo a casa eso es lo que le importa punto no claro que tienes cara y mucha a venir a defender aquí esto como si

el beneficio empresarial tuviera un impuesto fuera que ibamos a restar la competitividad de las empresas pero qué de qué estamos hablando

precisamente para ayudar a la economía productiva de euskadi no para generar el patrimonio de algunos no no para ayudar el conjunto de la economía vasca y luego dice que el problema es el gasto

es el ingreso usted es verdad que están queriendo arreglar nuestros problemas a base de recortar los gastos menos derechos menos prestaciones menos servicios menos cohesión y están orgullosos están orgullosos de que venga mario draghi aquí y nos diga

pero a cuenta de qué a cuenta de rebajar los salarios a cuenta de que los trabajadores tengan menos derechos

en base a tecnología a innovación a investigación a ser más competitivos a ser más productivos

todas las partidas que procuran eso las han recortado a la mínima expresión no es mi modelo y luego vienen con los planes conjuntos

a que las haciendas forales comuniquen los datos de los contribuyentes y tardaron

al ministerio de sanidad y a las farmacias vascas para aplicar el copago es decir para luchar contra el fraude no ahora para aplicar el copago y los recortes

en veinticuatro horas pero el caso es que por mucho que se empeñen aquí no hay planes conjuntos

las inspecciones que se hacen y los resultados de los tres territorios en cantidades afloradas efectivamente recuperadas porque hay una diferencia entre lo que se dice que aflora de más de uno a diez de lo que efectivamente se recauda voy rápido porque ya veo que el tiempo bueno con eh bildu poco tengo que decir comparto buena parte de la filosofía no sé si en la concreción algunas de las cosas que ha expuesto aquí en

pero lo que no comparto y eso se lo tengo que decir es esa necesidad de la soberanía fiscal

soy partidario de ceder soberanía fiscal y de otras a europa para hacer una europa bien diferente a la que tenemos ahora

sino económicas sino fiscales sino de política social la europa que de verdad creo

revisen esa apelación permanente a la independencia como tabla de salvación de todos nuestros males porque en este caso es justo lo contrario

institucional de euskadi es el mejor del mundo mundial y es buenísimo y nos ha permitido esto y entonces por qué el propio lehendakari habla

deficiencias ineficiencias que tenemos que ir adaptando a la realidad de los nuevos tiempos también lo he hecho también lo he reivindicado en tres años pero bueno y nos ha dicho que

de lo más ya si nosotros también pero cómo lo vamos a hacer

usted decía que la prioridad es la recuperación de la economía vale

ese es el debate cuando estamos hablando de la reforma fiscal y cuando habla de certezas

es que yo no quiero estar cada dos por tres hablando aquí de esto

una vez en la que resolvamos definamos y acordamos este asunto de una vez por todas

decía que la armonización es absolutamente necesaria bueno pues armonicemos aquí aquí estamos todos no entiendo esa de

hagamos el acuerdo en este parlamento que tiene competencias para hacerlo porque me ha leído no sé qué norma o no sé qué reglamento yo le he leído el artículo trece

que los territorios que las diputaciones que las haciendas harán planes y dice

de lucha contra el fraude y además dice que pondrán en común todos los sistemas incluidos los informáticos es que lo dice la ley y no lo hemos hecho es un incumplimiento de la propia ley y por qué

y creo que hay que hacerlo y acabo ya decía el consejero de

que quiere la reforma para garantizar la suficiencia financiera de las instituciones y para ayudar a la economía podría compartirlo pero para mí

es un instrumento para que las instituciones hagan lo básico lo fundamental que es lo que decía antes

prestaciones públicas que son la garantía de la igualdad y de la solidaridad es para que las instituciones ayuden a la

la riqueza con crisis o sin crisis por eso repito esta no es una cuestión coyuntural es una cuestión de país y esa reforma que consiga una fiscalidad más justa más equitativa y más suficiente es una obligación para todos nosotros ese es nuestro objetivo nuestro compromiso para eso esta tarde

presidenta primer asunto señor lópez no me agrupe usted por favor con el partido popular para dar usted su réplica

me agrupe usted con el partido popular porque sabe que no compartimos prácticamente de lo que propone y de lo que no propone el grupo popular señor lópez usted gobernaba en diciembre del año dos mil nueve no he criticado únicamente las disparatadas decisiones en materia fiscal

sino las suyas o las que ustedes no quisieron aplicar no se centre únicamente

en concreto durante el año dos mil nueve mire usted lo que respondía la señora madrigal parlamentaria socialista

cuando trajimos aquí un debate de fiscalidad queda muy bien eso de decir que se incrementen los impuestos a quien más gana y eso señoría es una sublimación de lo obvio si tenemos en cuenta que en todos los sistemas tributarios modernos la progresividad y la equidad forman parte consustancial del sistema esta misma respuesta del grupo socialista es efectivamente la que podría haber dado perfectamente y digo después el grupo nacionalistas vascos pero ustedes fueron

a finales del año dos mil nueve los que decían a los que proponíamos

que no eran en absoluto necesarias y votaron en contra de la recuperación del impuesto sobre el patrimonio y de otras muchas propuestas que aquí se debatieron efectivamente luego

pero en diciembre del año dos mil nueve ustedes decían esto digo por hacer memoria histórica y ser justos señor damborenea usted habla de debate viejo inútil

ustedes no cambian incluso el grupo nacionalista vasco ya está hablando de que es necesario reformar la fiscalidad ustedes consideran que es un debate viejo inútil e irreal pues nosotros consideramos que es indispensable

antes usted dice en fin parlamentario de upyd propone

ahí están planteadas nosotros no vamos a presentar cincuenta y tres propuestas de resolución pero cuarenta y tantas sí

hombre upyd la supresión de los territorios históricos no hombre no bajen al grano de las propuestas concretas que hemos planteado y efectivamente planteamos la reforma del modelo institucional y fiscal vasco

de lucha contra el fraude fiscal y que se incrementen las inspecciones

las sanciones que se eliminen las sociedades de promoción de empresas

a las rentas de trabajo y que se analicen determinadas deducciones lineales y por lo tanto regresivas por supuesto que hemos planteado propuestas concretas

de euskadi etcétera y también hemos propuesto siempre lo hemos hecho que las competencias fiscales ahora resididas en las juntas generales

estén resididas en el parlamento vasco por aquello señor lópez de ceder soberanía y también de la fiscal

ceder soberanía fiscal a españa y a europa ustedes no están de acuerdo nosotros sí siempre lo hemos dicho señor damborenea qué propone usted proponga usted algo a parte de tener más hijos

usted lo que ha propuesto ha sido bajar impuestos y tener más hijos para resolver el problema fiscal que tenemos en euskadi no ha dicho nada más

sabemos el resto de propuestas del partido popular en fin las propuestas del partido popular conocemos cuáles son impulsar recortes sociales y amnistiar a los defraudadores eso es lo que ustedes han hecho en todos estos años no han hecho otra cosa

el señor rajoy pero debatan de los asuntos concretos

por fin todos dispuestos menos usted a debatir de fiscalidad puede haber propuestas más o menos acertadas pero en fin parece que su grupo es el único que no tiene

desarmonización y coordinación se habla mucho esta desarmonización y coordinación se produce no solo porque determinados partidos defiendan cosas distintas en cada territorio o no solo porque gobierne en cada diputación partidos políticos distintos sino por el propio foral que tenemos que permite que haya descoordinación y desarmonización y por eso proponemos cambiar el sistema para garantizar la mayor

falla el sistema el problema no es solo que haya diferentes gobiernos en cada una de las diputaciones el problema es el propio modelo que proponemos cambiar

por qué no quieren ustedes señores foralistas cambiar este modelo por qué no quieren impulsar un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal

anteponen los supuestos derechos de los territorios históricos

siempre lo han hecho esa es la base del foralismo poner por delante los derechos de los territorios históricos a los derechos de los ciudadanos pues no los derechos los tenemos

modificar radicalmente sin complejos el modelo fiscal

y el modelo institucional y por eso proponemos que las competencias en materia fiscal residan en este parlamento como paso previo para que puedan residir

y como paso previo para que avancemos hacia una sola política fiscal en el conjunto de europa esa es la propuesta estamos de acuerdo en algunos principios que aquí se enarbolan pero que luego nos aplican efectivamente hay que ceder soberanía hay que ceder soberanía

en materia fiscal es lo mejor para todos también para los vascos

una reforma fiscal integral estamos en lo de siempre por quéahora sí y antes no qué han estado haciendo estos años ustedes se autodenominan el primer partido político del país por qué no actuaron como tal durante los tres años y medio anteriores como realmente el primer partido político del país que tenía que haber sido responsable que se tenía

por qué no actuaron así por qué dijeron que no a las reformas fiscales absolutamente

por qué dijeron que no por qué ahora sí y antes no esa es la pregunta que tienen que responder

no tenemos ingresos suficientes y hay que recortar pero es que tenemos que recortar o dicen ustedes que hay que recortar porque

además de otros muchos cambios una reforma fiscal y ustedes no quisieron esa es la realidad por lo tanto nosotros estamos dispuestos a reformar la fiscalidad

algunos impuestos deberán subirse por supuesto que sí pero prioritariamente lo que hay que hacer es luchar más y mejor contra el fraude fiscal y desde luego reducir el enorme gasto superfluo que sigue existiendo a día de hoy en euskadi podemos hablar

podemos hablar de las empresas públicas semipúblicas etcétera podemos hablar de las embajadas o de las embajaditas podemos hablar del propio modelo foral que consume

recursos y que no sirven además para garantizar lo más importante que es el estado del bienestar las políticas sociales la educación y la sanidad

del grupo socialista proponen justo lo contrario de lo que han hecho ya he recordado antes lo que se nos decía a nosotros en diciembre

y desde luego el objetivo es al menos nosotros lo planteamos así la reforma del modelo institucional y fiscal vasco para hacerlo más razonable y más transparente el traslado de las competencias fiscales al parlamento vasco como paso previo a que sean trasladadas al congreso

una sola política fiscal en el conjunto de europa una lucha prioritaria y mucho más intensa contra el fraude fiscal incluyendo

de lucha contra el fraude fiscal y una política fiscal más progresiva más justa que la actual una política fiscal que garantice las políticas sociales

más recortes sociales para defender más igualdad más solidaridad más y mejor distribución de la riqueza más y mejor atención a los ciudadanos que menos tienen creo que ese tiene que ser el objetivo hablaba el grupo nacionalistas vascos de pacto fiscal que dé certeza

que le acabo de decir creo que eso es lo prioritario y efectivamente habrá que impulsar otro tipo de políticas también hay que reformar el modelo fiscal y además hay que reducir

todos estos años y que los seguiremos haciendo en fin efectivamente como decía al principio nosotros también presentaremos una batería de propuestas de resolución

entonces como usted comprenderá he venido a lo que he venido

yo he dicho en mi primera intervención que esto lo hemos debatido en los últimos tres años más de veinte veces bueno no es viejo es antiguo

pero lo dije el año pasado y el anterior y el anterior porque ustedes traen el debate a la única institución que no tiene competencias para aprobar nada útil en materia fiscal porque este debate ustedes no lo llevan ni al congreso de los diputados ni a las juntas generales señor lópez

si a usted le preocupa la fiscalidad que nos afecta que nos afecta tanto la que se aprueba en el congreso de los diputados como la que se

plantéelo en las instituciones competentes donde lo que se aprueba

no nos lo trae aquí por eso le dije el año pasado que era inútil

e irreal le he dicho que es irreal porque el problema de este país no es la fiscalidad no es cierto el problema de este país es el paro la crisis económica y el cierre de empresas

y como tenemos ese problema tenemos menos recaudación y me dice usted que usted no es zapatero pero se le parece mucho

pues no lo sé yo no le he visto le he visto a usted y a su partido trasladarlas miméticamente a las tres juntas generales empezando por los cuatrocientos euros y quitando el impuesto de patrimonio

usted y su partido no sé con qué medida fiscal del señor rodríguez zapatero no estaba de acuerdo usted me dice que es que nosotros como somos la derechona nosotros lo que creemos es que los grandes empresarios

se publica hoy en un medio catalán hablando del impuesto de sociedades

en el ministerio de hacienda se cuenta la anécdota de que cuando el anterior secretario de estado de economía josé manuel campa preguntó a su colega de hacienda carlos ocaña

este le respondió que ni se le ocurría y le explicó que el impuesto que salió en el congreso de los diputados después de su tramitación parlamentaria no tenía nada que ver con el que había diseñado hacienda e incluso se explica

acababa con la introducción de una nueva desgravación a cambio del apoyo de los grandes empresarios al gobierno de rodríguez zapatero usted

se benefician de la fiscalidad llevamos un año cambiándola se lo he dicho antes lo que no puede venirme en la replica es a decirme que es que la derecha del pp y tal nosotros somos los que este año

quitar las bonificaciones del señor rodríguez zapatero a las grandes empresas multinacionales españolas

esto no es que usted me dice el sistema fiscal es injusto

el que han creado ustedes en toda españa y aquí que lo han trasladado miméticamente y yo estoy de acuerdo con usted que es injusto y esas cositas nosotros ya las estamos corrigiendo donde tenemos capacidad de hacerlo no venimos aquí ha decir que hay que corregirlas no las corregimos donde tenemos capacidad de hacerlo

se lo he dicho antes está usted empeñado en vender una historia sobre el fraude fiscal de que es que las administraciones de hacienda no están conectadas es todo un desastre mire tiene un problema que luego hay algún socio que como usted es socialista

existe esa conexión y luego ocurre lo que ocurre que sí existe

la hacienda foral de bizkaia va a saber que usted tiene un piso en cádiz haciendo solo así porque existe

porque existe es decir no venda algo que no es cierto

porque salir aquí a decir lo contrario de lo que se ha hecho hasta ayer

su medida fiscal y mira que el gobierno vasco tiene competencias propias en materia fiscal que las tiene

que las ejecute y la única que ejecutó fue bajar del impuesto que grava el juego el de las tragaperras un

superimportante donde los hay en este país para que mejore la productividad empresarial

esa ha sido su medida fiscal de su gobierno suya yo le voy a decir

usted no dice que es que tiene un modelo distinto al nuestro y yo se lo dije el año pasado

no lo sé es que no sé qué modelo tiene usted cuál es su modelo el que

el que ha presentado en álava que no es el que ha contado aquí el que ha votado en gipuzkoa

el que votaron ustedes en el congreso cuál es su modelo fiscal

y sí sé porque dos años después sigo esperando su propuesta fiscal la del partido socialista después de aquella reunión con su gobierno y con su partido para que nos dieran el documento para poder estudiar y trabajar a ver si se podía llegar algún acuerdo

usted sale aquí viene hacer la demagogia que debe ser fruto de la izquierda aquí también estos señores nos vienen a hablar de fraude fiscal y luego presentan enmiendas en bizkaia para que se reduzcan las multas porque es que los que más incumplen sois la pobre gente que no sabe cómo hay que hacer la declaración

es que aquí la izquierda cuando hace un planteamiento de lucha contra el fraude fiscal unos señores nos dicen que hay que rebajar las sanciones y los otros nos dicen que hay que publicar a quién se le va a inspeccionar esa es su propuesta ese es su modelo

nuestro modelo no es ese nuestro modelo es el que en el estado se han incrementado las inspecciones un veinte por ciento se ha recaudado muchísimo más cuarenta por ciento más que último que el último gobierno del señor rodríguez zapatero de inspecciones fiscales

a alguien le preocupa eso si hace sus deberes cuando está gobernando evidentemente tiene sus beneficios y supongo que hoy terminaremos este debate luego creo que nos van a presentar ustedes seiscientos mil propuestas nos parece fantástico yo solo espero

que en los últimos quince años no lo he visto que el partido socialista de euskadi presenta esas propuestas en los tres territorios forales

de resolución que van a presentar hoy nada más y muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

bien señor lópez
yo a usted solo una mención igual que me ha hecho usted solo una mención sobre el mismo tema soberanía fiscal

la soberanía fiscal a europa cierta soberanía fiscal a europa o hablar sobre soberanía fiscal y me indica que

exclusivas y excluyentes yo tampoco creo en las soberanías excluyentes sin duda alguna pero para poder ceder soberanía a europa hay que tener toda la soberanía tener soberanía para poder decidir

algo yo tengo que tener solo un cachito pues mal vamos porque cederé un cachito de un cachito y entonces vamos mal señor lópez muy mal

tener la soberanía que nos corresponde en política fiscal

que es la que nosotros estamos reclamando y por lo tanto nosotros nos sentaremos y negociaremos con europa no se preocupe y si hay que ceder se cederá pero negociaremos nosotros

o el estado francés o quien proceda en nuestro nombre no esto de las sucursales

cederíamos nosotros negociamos nosotros porque sobre nuestra fiscalidad nosotros decidiremos

y al señor maneiro que también le preocupaba pues la respuesta le sirve igual

sobre las prioridades de la política fiscal recuperación económica y creación de empleo

y reactivación económica esos son los principales fines de la política fiscal ahora mismo o

es que no estamos hablando de solucionar un problema coyuntural estamos hablando de que la política fiscal

nosotros queremos una política fiscal justa solidaria equitativa progresiva una política fiscal que redistribuya la riqueza

porque ahora necesitamos salir de una crisis que lo necesitamos o porque tenemos que crear empleo que lo necesitamos pero es algo definitorio eta

eta pasadan egunean komisioan esan nizun arazoa ez dela hori cuál es el problema que ahora no medios financieros no tenemos dinero para poder financiar la actividad de gobierno por eso han llegado ustedes al convencimiento de que hay que cambiar la política fiscal

nosotros y nosotras lo que creemos es que la política fiscal es otra cosa y no es que la queramos cambiar porque haya actualmente un problema de financiación coyuntural

porque la política fiscal que tenemos es injusta y no está acorde con el estado de bienestar que queremos que queremos para nuestra ciudadanía y ahí está el problema son dos bases distintas para un problema común y ahí es donde tenemos que estar

entzutera y a la señora gorospe simplemente un par de apuntes a dos cosas que me ha dicho directamente a mí armonizazioa ez da aitzakia guztiz beharrezkoa da

yo no digo que la armonización sea una excusa digo que la utilizan como excusa la utilizan como excusa cuando las cosas no salen como ustedes quieren la utilizan como excusa

pero si queremos hablar de homogenización hablemos de homogeneización señora gorospe

enarbolar la bandera de la armonización para que ese territorio tenga que hacer lo que a uno en ese momento le parece lo idóneo

hainbatek aipatu izan dozuenez presio fiskala yo creo que es bueno recordar últimos tres años ha habido modificaciones fiscales para incrementar la presión fiscal en el dos mil nueve dos mil once dos mil doce y las reformas

algunas por ejemplo apoyadas por el partido socialista claro que ha habido caída en la presión fiscal pero esta caída obedece fundamentalmente

de la actividad económica dos recesiones económicas en cuatro años y si no hay de dónde recaudar no se puede recaudar les haremos un análisis de la recaudación de tributos concertados en la comunidad autónoma del país vasco en el periodo dos mil cinco dos mil doce viendo la evolución de la recaudación de tributos en este periodo se pueden sacar varias conclusiones objetivas

en el dos mil doce en la comunidad autónoma estamos en unos niveles de recaudación similares en euros al dos mil seis la recaudación de tributos directos sobre los que tenemos competencia normativa crece

un once coma nueve por ciento sin embargo la recaudación de tributos indirectos sobre los que no tenemos competencia normativa cae un nueve coma seis por ciento incluyendo subida del iva

que esta caída de la recaudación provoca en los recursos públicos no están motivados

sino por la caída de la actividad económica provocada por la crisis los impuestos indirectos son el termómetro de la actividad que genera

es la causante de la caída de la recaudación de los impuestos indirectos y como consecuencia de toda la recaudación y es importante que lo tengamos claro

murrizketak egiten gipuzkoako foru aldundia recortes de bildu en la diputación de gipuzkoa

volver a insistir y quiero recordarle que nosotros no gobernábamos que nosotros no liderábamos que eran ustedes quienes estaban gobernando y no nos hagan responsables a nosotros de su inacción

fueron incapaces de hacer la situación económica encontrada por este gobierno y los recortes a las cuentas públicas que en consecuencia

únicamente de quién gasto más de lo que tenía y además ustedes recurrieron a la deuda pública para cubrir incluso el gasto corriente

de eso sí que se les alertó desde estas filas desde las filas del grupo nacionalistas vascos

del pnv que no ha gobernado en estos últimos años del pnv

hablaba usted de errores errores por ejemplo en no cargar la presión fiscal más sobre los que más tienen pero también aquí se habla de errores en el tema de desahucios de errores en el tema de pensiones en las decisiones que se han adoptado me parece y luego sin embargo nos dice que nosotros le estamos cambiando

y no cambiamos la historia señor lópez se la voy a leer rápidamente gatzagaetxebarria nosotros no le tenemos miedo a este debate pero entendemos que la competencia establecer mantener y regular corresponde a las instituciones forales

que los planteamientos deben hacerse en el foro correspondiente lo mismo que hoy les hemos dicho buscar fórmulas donde puedan existir vacíos o beneficios fiscales no operativos lo mismo que hoy les hemos dicho como hemos hecho ahora como se pueden hacer con el impuesto de sociedades y con el impuesto de la renta de las personas físicas como hoy les hemos dicho os releo unos párrafos de nuestro compañero también

de la búsqueda de la reforma del sistema tributario va a ser partícipe de ese objetivo desde el respeto de los ámbitos competentes lo mismo que hoy les estamos diciendo

estamos dispuestos sí a buscar acuerdos para hacer país no para deshacerlo

y lo primero que le propongo es buscar un acuerdo para hacer una profunda reforma fiscal creo

para hacer lo que usted en ese debate propuso

nos emplearemos a fondo para el acuerdo estamos dispuestos a hacer cesiones como creemos que el resto también tendrán que hacer porque el acuerdo

de que todos dejemos algún pelo en la gatera eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea orain eten egiten da